guztioi es cierto que este tema que vamos a tratar se ha tratado en muchas ocasiones en esta cámara pero creo que hay que reiterarlo porque

si no pudiera parecer que con decir no vamos a cumplir el mandato parlamentario el cinco de febrero de un plumazo desaparecieran los problemas que

esta moción en el que interpelé a la consejera de educación y política lingüística si iba a cumplir el mandato del cinco de febrero cuando la mayoría parlamentaria pidió

ella contestó que no como contestó que no el lehendakari en un claro desprecio a la voluntad a esta cámara yo decía

que e i te be desde la llegada del lehendakari urkullu y de maite iturbe y su equipo vive el peor momento de su historia la dirección y la plantilla están enfrentadas las

las audiencias de televisión por mucho que intenten enmascararse no despegan y la gestión laboral es a todas luces desastrosa hubo la primera huelga

absoluto siete días y apagón casi general y una nueva huelga

la dirección se negó a programar indicativos durante las emisiones de radio para informar el motivo de esa huelga en un claro ejemplo de lo poco que le importa a

ser un servicio público al servicio de los ciudadanos una vez más se demuestra

y su intención de que las radios públicas no estén al servicio de los ciudadanos sino al servicio de intereses partidistas a nosotros nos parece que no es de recibo tener a los trabajadores protestando en la calle un día sí y otro también por lo visto

le parece que sí protestando por la vulneración de sus derechos porque el resultado de la convocatoria pública de empleo es que personas casi setenta algunas con muchos años trabajando en el ente

porque nos encontramos señorías con una ope o con una convocatoria de empleo público que paradójicamente supone que lejos de crear el mismo se va a destruir

hemos dicho en muchas ocasiones por la necesidad de regularizar contratos pero como hemos dicho desde entonces esta regularización ya se había producido ya estaban regularizados

como dijo la directora en su última comparecencia la plantilla se come dos tercios del presupuesto y hay que reducirla esa es la única intención de la dirección no la regularización de la plantilla no señorías simplemente reducir costes reducir costes para que no se tenga que volver a inyectar otros cuatro millónes de euros para evitar que el balance fuera deficitario y a este grupo le puede parecer bien que se reduzcan costes claro que sí pero que se haga teniendo en cuenta todos los parámetros que se haga de forma valiente y haciendo frente a las consecuencias y no utilizando al eslabón más débil

desde la primera sesión del consejo de administración en el que se votó esta oferta de empleo público supone un ere encubierto una reducción de plazas y era sorprendente que se quisiera vender como creación de empleo lo que no es más que una reducción del mismo una convocatoria como decía

los derechos de los trabajadores cuya relación laboral con el ente ya había sido declarada inspección laboral la convocatoria ha sido impugnada por la abogacía del estado que no ha fallado a favor de e i te be como se nos quiso hacer ver el otro día en el consejo de administración no lo que ha dicho es que el recurso se presente en la jurisdicción social solo cambia el terreno de juego el caso es que deberá ser trasladado en los próximos veinte días al juzgado de lo social que tendrá que analizar la legalidad de esta convocatoria pública de empleo y además existen otros dos procesos pendientes impulsados por los trabajadores

qué va a pasar si finalmente esas setenta y nueve personas tienen que ser readmitidos a los tres millónes que hubo que pagar a la seguridad social ahora va a haber que añadir más fondos se va a volver a hacer otro ere con más plazas una y otra vez como hemos dicho aquí se negó que era un ere una y otra vez los trabajadores

pero en la reunión de enero pasado como dije aquí hace quince días ya las cartas se pusieron sobre la mesa y el ere quedó al descubierto eso sí con un apellido

instrumental si como dije porque es un instrumento para echar a la calle a unas personas que tienen una relación

porque como he dicho muchas veces esto supone que muchos trabajadores se vayan a la calle como digo acudir al eslabón más débil ahora sí

de gastos excesivos de personal de sostenibilidad de necesidades de la radio y la pregunta que cabe hacerse es por qué solo se analizan las necesidades de la radio por qué no se estudia toda la plantilla por qué no se estudian los contratos con las productoras por qué no se estudia la posibilidad de optimizar dichas plantillas qué va a pasar

pasen también a ser indefinidos no fijos luego ahora la plantilla de e i te be net se ha duplicado se va a poner otro parche haciendo una convocatoria de empleo para regularizar de nuevo a esos trabajadores y también

nosotros pedimos aquí su cese todos los grupos pero también los trabajadores lo han pedido porque después de hacer una consulta

mayoría dijese que la dirección de e i te be no podía seguir al frente

y no tiene el apoyo del parlamento parece como dije que en algunas ocasiones las decisiones de esta cámara deben ser atendidas a pies juntillas

en otros casos no y quien más debiera atenderlas que es el gobierno que sale de este parlamento señala que no va a cumplir una decisión del mismo y aduce que la oposición no hace ninguna propuesta de dirección

en cumplimiento de la iniciativa presentada por este grupo y aprobada se da cuenta en esta cámara

dirigido a aquellos que directamente el gobierno decide que no va a cumplir

de la falta de propuesta de la oposición son ustedes

los que cumpliendo el mandato de esta cámara tienen que cesar a la dirección actual y hacer la propuesta de una nueva dirección vista la pérdida de confianza de la actual no pasen la pelota al tejado de la oposición pero como digo no parece que estén dispuestos a hacerlo y se escudan

y en la distinta naturaleza de las razones para votar favorablemente y es verdad que las razones pueden variar pero la decisión fue la que fue

en nuestro caso además de la nefasta gestión laboral también

la línea que lleva etb en relación con el contenido de la programación y su falta de correspondencia con su carácter de servicio público como he dicho en muchas ocasiones los temas de actualidad de e i te be además de ser publirreportajes de las bondades de todas y cada una de las decisiones del gobierno vasco y de crítica de todas y cada una

se reducen fundamentalmente a aquellos temas que figuran en la agenda de los grupos nacionalistas

los temas que día a día se debaten el tratamiento de las iniciativas es diametralmente opuesto si su paternidad corresponde al partido nacionalista vasco o a bildu en algunos casos

en referencia habitual a la hora de diseñar los contenidos de información y debate sin embargo cuando

provienen de grupos no nacionalistas el tratamiento es radicalmente diferente y además los contenidos de la cadena no reflejan los problemas de los vascos porque cuál es la principal preocupación de los vascos la principal preocupación de los vascos en estos momentos en cualquiera de las encuestas que uno mire es el empleo y la recuperación económica

pues informar a los ciudadanos y ocuparse de esos temas que interesan

es un medio pagado con el dinero de todos y por lo tanto todos deben verse reflejados con independencia de su ideología pero como digo eso no ocurre en este momento en e i te be y lo he dicho muchas veces y lo quiero repetir para que quede bien claro si eres nacionalista eres un espectador de primera categoría si no lo eres claramente eres un espectador de segunda la prioridad en los contenidos y en el enfoque responde no a criterios de actualidad sino a criterios de oportunidad política más que de oportunidad política de oportunidad partidista para beneficiar siempre

del debate del estado de la nación por ejemplo entendemos

está haciendo dejación de su labor de informar para pasar a adoctrinar

el partido nacionalista vasco no tiene que esperar a que pasen las elecciones municipales para decirnos cuál es

el que tienen implantado en e i te be una e i te be además también en la que el tratamiento del terrorismo como dije y lo quiero repetir

y la cobardía moral nos encontramos con que

que debería hacer e i te be para hacer realidad un relato sobre el terrorismo en el que la memoria fuese una herramienta esencial para deslegitimación total del mismo

selectiva pero sin embargo en e i te be esto no sucede no sucede

del daño causado y la dignidad de las víctimas desde e i te be se busca cualquier aniversario para justificar la misión de una película de una programación

siempre y cuando el tratamiento a las víctimas de eta y al terrorismo de eta estuviera equiparable pero no es así no es así como he dicho muchas veces mientras que

sin embargo películas dedicadas al terrorismo de eta nunca aparecen mientras asier eta biok aparece en prime time películas como mil novecientos ochenta

esa es la deslegitimación del terrorismo de eta que en este momento hace e i te be por no decir por no insistir aquí en la intervención

debatea haciendo las afirmaciones que hacía y que después de preguntado aquí después de vuelta a llevar el tema al consejo de administración solo conseguimos de la directora de e i te be que dijese que va a cumplir el plan estratégico en lo relativo a deslegitimación del terrorismo pero ni una palabra de censura a lo que le parecía la intervención de mikel

creo que no estaría mal que el gobierno vasco echase mano y e i te be echase mano de la ley cuatro barra dos mil ocho de reconocimiento y reparación de las víctimas del terrorismo aprobada en este

comprometiéndose a promover campañas de sensibilización y formación de los profesionales de la información a fin de fomentar la defensa de los derechos y de la dignidad de las víctimas y

esos errores o esas meteduras de pata tan infames siempre con las víctimas del terrorismo de eta porque o bien la dirección de e i te be

otro lado o lo que sería más grave porque está de acuerdo en algunos supuestos con lo que se hace por lo tanto desde todos los aspectos que se mire

aspecto como hemos dicho existen peticiones desde todos los ámbitos para su sustitución pero la más importante es la que se produjo en esta cámara el cinco de febrero en el que la mayoría parlamentaria dijo que no podía seguir en su puesto

eso le corresponde al gobierno o que pasa que si pedimos el cese

tenemos que decir qué consejero tiene que sustituirle creo que eso no es de recibo eso como digo es pasar la pelota al tejado de la oposición

no se tiene la suficiente valentía para tomar una decisión que la cámara y suficiente respeto a esta cámara para tomar una decisión que la cámara le ha pedido que tome

qué iban a hacer después de esto nos quedó muy claro su respuesta pero hoy le volvemos a pedir que respete la decisión

upyd una enmienda transaccional que tiene dos puntos dos concretos el primero de ellos

y el segundo que la nueva dirección de e i te be se comprometa a convertir a e i te be en un verdadero servicio público y que cumpla con aquello que viene establecido en el plan estratégico

sí gracias presidenta buenos días a todas y a todos señoras y señores consejeros señor lehendakari

respete lo que diga este parlamento sino que cumpla lo que este parlamento dice y la verdad es que se acumulan ya las iniciativas parlamentarias incumplidas por parte de este gobierno pero es que esta de la que estamos hablando es esencial y es extraordinariamente importante

y no sé por qué tenemos que volver a tratar un asunto que ya ha sido tratado este es el asunto el pasado día cinco de febrero el parlamento vasco pidió la destitución de la directora general de e i te be su cese le retiró la confianza el parlamento la eligió en un momento determinado como consecuencia de un pacto político que nunca ha sido explicado por cierto

y el partido socialista de euskadi y tiempo después en concreto hace dos semanas este parlamento dijo que no quería que esta persona siguiera siendo directora general de e i te be usted por lo tanto señor lehendakari tiene que cumplir tiene que su confianza en la directora general de e i te be ha perdido la confianza del parlamento no cumple por lo tanto los requisitos mínimos para seguir siendo directora general de e i te be y lo que usted ha demostrado durante las últimas dos semanas es que desprecia absolutamente los mandatos de este parlamento yo mismo también le pregunté

este mandato parlamentario porque nos temíamos lo peor y efectivamente usted dijo que no

absolutamente insostenibles no se puede decir que usted

de que ha habido diversos grupos políticos que han firmado una transaccional y que la firma de esa transaccional es consecuencia de posturas diferenciadas entre esos grupos políticos es insostenible porque todos dijimos al menos una cosa

una cuestión que la directora general de e i te be no puede seguir siendo directora general de e i te be y todos los grupos sin excepción dijimos también muy claramente que la dirección

está al servicio del partido nacionalista vasco no lo dijo solamente upyd lo dijimos todos los grupos luego evidentemente cada uno puede explicar mejor sus razones y sus divergencias

pero en eso coincidimos señor lehendakari todos los grupos de la cámara menos el partido nacionalista vasco que es evidentemente el partido político al que sirve la actual dirección general de e i te be por lo tanto

esta nueva transacción que hemos firmado en este caso con el partido popular

con el grupo socialista hace un doble llamamiento a la señora iturbe para que se de cuenta que no goza ya de la confianza de este parlamento

de que este parlamento comience a dirigir sus miradas hacia su persona porque usted es el máximo responsable de mantener en su cargo a una persona

de este parlamento en fin llevamos tiempo dando

suficientes que explican que esta persona no puede seguir en su cargo fundamentalmente al menos por parte de upyd porque está al servicio del gobierno vasco y está

nacionalista vasco por lo tanto lo que usted tiene que hacer y ya cansa tener que repetir las razones en fin por las cuales pedimos esto lo que usted tiene que hacer es pedir el cese de la directora general de e i te be retirarle su confianza

se iría rápidamente se tendría que haber ido ya porque ella ha visto que no goza de la confianza de este parlamento hemos explicado que e i te be ha dejado de cumplir si es que algún día cumplió los principios fundamentales debería seguir objetividad informativa neutralidad ideológica respeto al pluralismo político veracidad imparcialidad profesionalidad

dos años las razones se nos acumulan cómo se tratan los temas el momento en que se tratan los temas el lenguaje que se utiliza el modo de narrar lo que se cuenta las tertulias los tertulianos los moderadores los teleberris los programas informativos

de cosas que hacen insostenible el mantenimiento de la actual directora general de e i te be porque ella es responsable pero usted es responsable último usted responsable de que se mantenga esta situación por eso hemos llegado a esta enmienda transaccional

nuevamente pueda ser aprobada por una mayoría de grupos dice la enmienda del grupo nacionalistas vascos o define en esta enmienda a e i te be

como uno de los pilares fundamentales del autogobierno vasco el asunto es que e i te be es uno de los pilares fundamentales del nacionalismo vasco no puede ser tiene que estar al servicio del conjunto de la ciudadanía o es que acaso lo que diga este parlamento no vale para nada no vale para nada no estamos diciendo que hay una inmensa mayoría que no nos vemos representados en la actual dirección general de e i te be y en lo que hace cada día e i te be que no es cosa ya únicamente de upyd no una mayoría de grupos ustedes están ciegos están sordos

no se dan cuenta de esto creo que

tener que insistir en esta cuestión son muchas cosas las que se necesitan desde luego en el corto plazo que se cambie a la directora general de e i te be

la ley de creación de e i te be nosotros hace dos años casi ya presentamos una iniciativa instando al gobierno una modificación de esta ley para que tanto la dirección general de e i te be como el consejo de administración de e i te be pueda ser elegido de otro modo distinto para asegurar la profesionalidad de todos sus miembros que es lo que hay que garantizar ahora observo en los últimos días que algún otro grupo ha presentado en rueda de prensa

hace ya dos años se trata de tener profesionales al servicio del conjunto de la sociedad no a representantes políticos que van a defender a un determinado partido político

al gobierno nosotros ya lo defendimos y evidentemente esa tarea también queda pendiente modificar la ley para corregir el modo en que se elige a la dirección general de e i te be y a los miembros del consejo de administración para que no sean comisarios políticos o representantes de los distintos partidos políticos también lo defendimos hace dos años el resto de grupos votó en contra todos votaron en contra pero esa labor antes o después habrá que hacerla para tener el mejor servicio público

muy profunda sobre qué e i te be queremos para el futuro nosotros pensamos que hay que redimensionarla y hay que hacer un cambio profundo en su estructura

pero que cumpla un servicio desde luego si va a estar al servicio del partido nacionalista vasco

tengamos que pagar todos los años ciento diez millónes de euros que se lo pague directamente el partido nacionalista vasco o cada uno de sus afiliados esas son

de manera urgente la destitución de la actual directora general de e i te be modificar la ley para que pueda ser elegida esa dirección en base a un procedimiento limpio y puedan ser elegidos los mejores profesionales y

sobre qué es exactamente lo que queremos incluido obviamente su redimensionamiento en fin esperamos que

observe qué es lo que dice cada uno de los partidos políticos y esperamos que el lehendakari respete al parlamento y cumpla los mandatos parlamentarios el del cinco de febrero también

respecto al segundo punto de la moción del partido popular señora llanos escuchándola

a la realidad socio política del país el partido popular pretende que sea e i te be la que se adecue a las posiciones políticas del partido popular

porque se están alejando cada vez más de sus demandas y no solo en lo político no solo en lo que

y también en lo social esto lo quería dejar claro porque nosotros no compartimos la razón de ser de su segundo punto no compartimos aunque podríamos decir que nosotros también somos críticos con la línea editorial del tratamiento informativo de e i te be

que se censura al eliminar un debate porque el unionismo se haya quejado nos sorprende también

tengan menos espacio en e i te be que uno en descarga que bidegi a e i te be le quede más lejos que los eres de andalucía o la familia pujol y que también nos resulta sorprendente poder dar una noticia sobre hiriko sin mencionar al pnv pero e i te be lo consigue

aun así creemos que cuando abordamos la cuestión del tratamiento informativo de la línea editorial

no se están refiriendo a lo mismo de todos modos la real academia de la lengua dice limpiar fijar y dar resplandor a la lengua castellana creemos que

ocurre algo similar pero con el pnv albistegintzan eitbk indartu egin behar ditu profesionaltasuna

andrea egun on guztioi lehendakari jauna sailburuok legebiltzarkideok evidentemente vamos a votar en contra de todas las propuestas presentadas

no existen razones objetivas para pedir ningún tipo de relevo porque el actual equipo de la dirección de e i te be está desarrollando

notable y ahí están los datos y porque además teniendo en cuenta la inexistencia de una alternativa sería una inexplicable irresponsabilidad institucional dejar sin dirección a e i te be cosa que evidentemente no vamos a hacer por mucho lenguaje insultante arrogante que se utilice

kultura baloreak eta bizitza estiloak tresna ekonomiko zein politiko eta sozialak dira si esto es así y nosotros creemos que lo es las naciones unidas ya establecieron allá por el año mil novecientos setenta y tres

de los medios de comunicación adecuados que le permita informarse sobre su propia realidad y sobre la realidad que le circunda

dicha información única y exclusivamente por medios de comunicación que no sean propios con esto quiero decir que en un mundo cada vez más globalizado

de sistemas y de las tecnologías de la información la digitalización y todos sus derivados como las nuevas formas de consumo de productos audiovisuales donde los modelos culturales e idiomáticos dominantes

se imponen por su poderío económico y cultural que los vascos podamos disponer

de un grupo de comunicación multimedia televisión radio

que sea de carácter público que sea de calidad fuerte y competitivo que impulse el euskera y la cultura vasca y que esté hecha por nosotros

al objeto de ofrecer a nosotros y al mundo la visión e interpretación que hacemos nosotros los vascos

es básico para no ser literalmente barridos por estereotipos y modelos culturales e informativos externos egin dezakegun galdera

un país pequeño como euskadi sin e i te be sin una televisión propia tendría muy serias dificultades para tener una ventana abierta al exterior y hacerse visible desde el punto de vista cultural lingüístico económico social o deportivo sin e i te be

las razones que impulsaron su creación siguen vigentes

necesita grupos públicos de comunicación fuertes los países emergentes en el mundo están fortaleciendo sus sistemas públicos en este sentido e i te be juega un papel crucial de servicio público de promoción innovación y en definitiva de instrumento para la construcción de marca de país en un entorno de la sociedad de la información que vislumbramos

bukatzen zuen queremos poner en valor nuestra contribución de servicio público como empresas públicas

una última cuestión que me parece importante subrayar e i te be es un grupo multimedia apreciado y bien valorado por la sociedad vasca

e i te be ha cumplido estos años con notable los fines señalados por la ley de creación que la considera como un instrumento capital para la información y participación política de los ciudadanos vascos así como un medio fundamental de cooperación con nuestro propio sistema educativo y de fomento y difusión

el fomento y el desarrollo del euskera ukaezina da jaun andreok helburu horiek lortzeko eitb erabat

de toda una serie de datos que creo que avalan todo lo que acabo de decir y específicamente la última consideración en relación a lo que opina la sociedad vasca

izaera podríamos reproducir aquí el debate sobre el ere podríamos reproducir los debates sobre la mala gestión de los recursos humanos o sobre la paulatina pérdida de audiencias o sobre la política de contrataciones o sobre la deriva de unos contenidos orientados a una parte de la población exclusivamente y que no quede dudas seguimos criticando

de e i te be una línea que consideramos que se identifica plenamente con el gobierno nacionalista y con el nacionalismo en general y que nadie se lleve engaños seguimos criticando rotundamente la falta de sensibilidad con las víctimas del terrorismo que se reflejan en muchas de las actuaciones

behin eta berriz aztertuko dugu porque el debate en torno a e i te be y la actual gestión se ha querido situar deliberadamente en un plano político es en esa sección en la que aparece en los diferentes medios de comunicación y ha sido precisamente al partido nacionalista a quien le ha interesado

haciendo como suele hacer habitualmente victimismo y acusando a la oposición de querer desgastar al gobierno por esa vía

lo que ha ocurrido en los últimos meses no es más que consecuencia de lo que ya habíamos advertido reiteradamente en esta cámara y en los medios de comunicación

refrendar la propuesta del gobierno para la dirección general lo hicimos con unas consideraciones sobre la línea editorial pero también sobre la necesidad de abordar una reflexión en torno

entre otras cosas porque las limitaciones del actual modelo se habían demostrado con crudeza ya en el anterior mandato cuando estalló la crisis económica con toda su crudeza y se redujeron

corrían nuevos tiempos y considerábamos que había que adaptarse a ellos y por eso excluimos expresamente ese compromiso de reflexión en nuestro programa electoral

de una ocurrencia de última hora sino como digo ya en el programa electoral para las elecciones autonómicas el partido socialista incluimos una reflexión profunda sobre la deriva sobre el futuro de la radio televisión pública vasca sin embargo

de que ella fuera directora por eso comunicamos y lo dijimos públicamente que nos sentíamos desvinculados de aquel acuerdo y comunicamos que los socialistas seguiríamos trabajando

en todos los ámbitos eso es lo que anunciamos hace un año eso

una reflexión sobre el modelo de la radio televisión pública vasca no se nos ha ocurrido ayer lo dijimos ya en el mismo programa y lo reiteramos como digo

en todos los debates que se han venido produciendo al respecto en esta cámara sabemos que es un asunto complejo y que tiene que contar con el más amplio consenso político sindical y social

no se pueden seguir poniendo excusas todos los ciudadanos todas las ciudadanas de cualquier sensibilidad política sentirse reflejados en e i te be todos y todas deben sentirla como un servicio público como un servicio propio elemento fundamental de nuestra autonomía nosotros ya estamos socializando nuestra idea

no lo hemos hecho tampoco en este parlamento y hoy necesita ser actualizado este debate necesita ser actualizado esta reflexión

sobre el futuro de e i te be entre otras cosas e i te be necesita que sus estructuras empresariales y de recursos humanos se adapten a las demandas actuales tanto tecnológicas como de consumo audiovisual necesita ampliar audiencias y buscar al público euskaldun que le rehúye necesita ser generador

aporte nuevos ingresos porque exporta productos en lugar de ser replicante de formatos o fabricante de programas de difícil encaje más allá de las fronteras de euskadi necesita

bajo el control que requiere el uso de fondos públicos y del servicio que debe prestar al conjunto de los ciudadanos en resumen nos hace falta una e i te be

que responda a la nueva realidad social vasca al mayor número de vasco hablantes que incorpora a los jóvenes que se adapte a las nuevas formas de consumo audiovisual que sea generador

audiovisual vasca que hoy está dispersa y que no tiene el suficiente potencial queremos

que preste un servicio público y que lo haga con criterios de eficiencia con el uso del dinero público por todo ello es para todo ello para lo que se necesita adaptar su estructura empresarial

para eso necesita profesionalizar su dirección y mejorar los mecanismos de control de su gestión para eso necesita adaptar todos los recursos humanos con formación de los trabajadores y negociación con sus representantes

para eso necesita ofrecer a sus trabajadores fórmulas de desarrollo de su carrera profesional y todo ello requerirá de reformas legales y de mucho diálogo pero sobre todo

del medio e i te be hoy reiteramos nuestra desconfianza en la actual dirección creemos que no es la adecuada

creemos que no está respondiendo a los retos que tiene hoy mismo y que tampoco tiene una capacidad para responder en el futuro y creemos que el gobierno

esa necesidad de cambio de momento relevar a la actual dirección y replantearse sus contenidos sería un buen comienzo hoy para seguir mañana con una revisión integral
de este servicio público muchas gracias eskerrik asko unzalu jauna

gracias de nueva señora presidenta bien cuando hemos traído este debate aquí

es verdad que es un debate que ya se ha realizado

cuando se realizó ese debate en el que se pedía una cuestión muy concreta después se preguntó al gobierno

si se iba a cumplir esa proposición ese acuerdo que aquí se tomó y directamente el gobierno

que iba a hacer caso omiso de la mayoría parlamentaria que iba a hacer caso omiso y por eso nosotros hemos traído aquí y hemos puesto encima de la mesa la necesidad de cumplir sobre todo en cuestiones tan importantes como esta lo que la mayoría de este parlamento ha dicho lo que pasa es que para hacer cumplir eso hace falta decir por qué es importante por qué en esta cuestión concreta

que se cumpla el mandato parlamentario y explicar eso nos lleva a volver al mismo debate que se ha producido aquí pero que debates reiterados en esta cámara ha habido en muchas ocasiones

en el mismo periodo de sesiones creo que no es algo absolutamente extraño aquí

se habla de la realidad del partido popular y que si la realidad que refleja e i te be mire la realidad que refleja e i te be lo hemos dicho en muchas ocasiones creo q como medio público en algunas cosas estoy de acuerdo con usted en algunas cosas estamos de acuerdo que se prefiere

somos la arcadia feliz jamás sale las decisiones del gobierno vasco son publirreportajes las críticas que el resto de los grupos hacemos al gobierno vasco aparecen de forma absolutamente

las intervenciones del

en una cartulina por el presentador eso es equidistancia no en absoluto

pero es que cuando nosotros pedimos la comparecencia de la señora directora de e i te be en esta cámara

que no se tenía que tener en cuenta para nada y en el sociómetro

en los dos primeros puestos claramente está el paro y la recuperación económica

bastante más abajo está el interés por el nuevo estatus bastante más abajo y a eso se dedican monográficos en la cadena monográficos

la realidad no es la euskadi de los siete territorios no es esa les gustaría pero no es y navarra

y la realidad no son las portadas de gara o las portadas de deia no

que es lo que se utiliza habitualmente y desde luego nosotros

se ha entendido que estamos utilizando la petición de cese de la directora de e i te be como un instrumento de oposición política no

que se sustituyera a esta dirección y la nueva dirección siguiera en la misma línea como yo estoy de acuerdo con usted no sirve de nada que se suprima el programa debatea

que lo que no hay que hacer es llevar a determinados contertulios que defienden determinadas posiciones que son contrarias a lo establecido en el plan estratégico a determinados programas

no pasa exclusivamente por sustituir a la persona en la dirección ni pasa por suprimir un programa

por asumir que es un servicio público al servicio de los ciudadanos vascos no una televisión para el pueblo vasco como dice usted pero claro señor

es el pueblo vasco sinónimo de ciudadano nacionalista de ciudadano nacionalista y mire

pero desde luego en su primera intervención me ha sorprendido porque ni tan siquiera ha defendido

a contar la importancia que tiene para un pueblo tener su propia televisión

sí porque cuenta una realidad a la medida del pueblo nacionalista a la medida del pueblo nacionalista pero es que da la casualidad de que ese medio público que nosotros no ponemos en duda que tenga que existir

nacionalistas y no nacionalistas y todos nacionalistas y no nacionalistas

en esa televisión y en este momento no sucede eso y si me va a decir

vamos peor y en temas económicos el déficit cero sabe por qué es porque hay inyecciones del gobierno porque no

con publicidad ni se tienen recursos públicos y no se llega al final se necesitan inyecciones ni desde ese punto de vista la gestión de la actual dirección
se sostiene nada más muchas gracias eskerrik asko llanos andrea

arrogancia la suya señor uribe dice usted no existen razones objetivas para pedir su cese bien es la opinión de veintisiete de setenta y cinco parlamentarios de esta cámara es su opinión es la opinión del grupo nacionalistas vascos que está en minoría es su opinión respetable pero minoritaria

objetivas para pedir su cese es su opinión por lo tanto

dice usted que la dirección ha realizado un trabajo notable según usted según el grupo nacionalistas vascos según la minoría de este parlamento

considera que ha sido un trabajo desastroso y por eso pedimos su destitución ni más ni menos pura democracia y juego de mayorías y de minorías respetable su opinión pero ya digo que en todo caso no es lo que opina la inmensa mayoría de esta cámara por lo tanto arrogancia y prepotencia la suya creo que aquí nadie ha faltado al respeto ni a usted ni al grupo nacionalistas vascos hemos dado datos y hemos dado nuestra opinión y hemos explicado por qué pedimos su cese dice que no hay alternativa es que es el gobierno el que tiene que presentar una alternativa lo que está claro es que esta directora general de e i te be ya no cuenta con el apoyo de este parlamento la eligió

nadie pretende suprimir ni eliminar e i te be nadie lo que queremos es que sea un ente al servicio del conjunto de la sociedad vasca no que sea un instrumento al servicio del partido nacionalista vasco

queremos que sirva a la ciudadanía en general esto es lo importante y lo que reclamamos dice usted que e i te be quedaría descabezada

e i te be se quedará sin director general a partir del próximo viernes leo la noticia del nueve de enero de dos mil ocho ojo porque el director general de e i te be

pide al consejo de administración comprensión ante la situación

a partir del viernes las funciones de director general serán repartidas entre cuatro altos cargos

hacia la situación que su marcha va a crear fuentes de e i te be precisan que la gestión queda garantizada esto ocurría en el año dos mil ocho

la situación del ente será equiparable se decía a la que se produjo cuando el anterior director general

dejó el cargo en mil novecientos noventa y nueve agregaron dichas fuentes e i te be ya estuvo entonces sin máximo mandatario y por lo tanto podrá

decía el que iba a dimitir director general de e i te be el señor ortuzar otro dato más que echa por los suelos sus argumentos

nos va a dar cuenta de lo que piensa la sociedad vasca esto es lo que ha dicho el señor uribe y entonces los parlamentarios vascos en el parlamento tenemos que esperar a que el señor uribe

para saber qué es lo que piensa la sociedad vasca esto no es arrogancia no es prepotencia no está aquí representada la sociedad vasca no está aquí representada qué vale más una encuesta que lo que dice este parlamento este parlamento ya ha pedido el cese de la directora general de e i te be no me traiga usted una encuesta esto es la vida real aquí está presentada la ciudadanía y la inmensa mayoría

a esta persona no me traiga por lo tanto ninguna encuesta respete por lo tanto a la sociedad respete al parlamento no nos traiga ninguna encuesta

respete por favor el parlamento y lo que este parlamento está diciendo y lo que está diciendo cada uno de los grupos no solamente el voto definitivo sino los argumentos

pensamos que e i te be está al servicio de su gobierno y al servicio del partido nacionalista vasco esto es lo que llevamos diciendo

y para terminar creo que el partido socialista de euskadi nos debe una explicación a este parlamento y al conjunto de la sociedad en relación a la elección en su momento de la actual directora general de e i te be ustedes apoyaron a esta directora general de e i te be tienen que explicarlo qué pacto hubo por qué y para qué porque ustedes quieren hacer una reflexión ahora y antes

no estaba ya en su programa político según ha explicado por qué se eligió a la señora iturbe qué es lo que había detrás ahora hay que reflexionar

decidieron porque estamos pagando las consecuencias ahora y ahora quieren hacer una reflexión integral ahora y antes qué es lo que pidieron a cambio del voto

la sociedad se lo agradecería por razones de transparencia queremos saber qué es lo que el partido socialista de euskadi pidió al partido nacionalista vasco para votar a favor de la señora iturbe esa es la explicación también que queda pendiente señor urkullu usted se ha vuelto hoy a enfrentar a los ertzainas que estaban manifestándose en la puerta

algo les ha dicho maneiro amaitzen joan mesedez usted es una persona sensible no le gusta que le digan determinadas cosas

al mandato de este parlamento escuche a este parlamento respete a este parlamento si efectivamente usted es una persona tan sensible eskerrik asko maneiro jauna

eskerrik asko señor maneiro le insisto que por mucho

irrespetuoso arrogante y descalificativo que habitualmente utiliza con todos y con todo la sociedad vasca como luego le reflejaré aprecia a e i te be y quiere a e i te be

no es habitual en usted un poco nerviosa y se le habrá ido un poco el lenguaje no se lo tomo en cuenta porque

ingresos vía publicidad y vía ingresos por lo que pueda alquilar en cuanto a sus instalaciones etcétera supongo que no pero el concepto lo utiliza mal habitualmente y bueno en otra ocasión o fuera de aquí ya intentaremos explicarle como ha hecho la directora general qué es eso del déficit cero pero usted lo utiliza

digamos que tienen la intención oculta de una pretendida privatización de todas las televisiones

en cuanto al partido popular y su postura en el conjunto del estado y ejemplos tenemos pero como usted dice

lo que me sorprende del partido socialista también es que tienen la rara debilidad de considerar a e i te be siempre al borde del abismo cuando están en la oposición

porque ustedes han estado en el gobierno estuvieron en coalición con nosotros y luego posteriormente la última legislatura en la anterior legislatura han estado gobernando en solitario con el apoyo del partido popular por supuesto que elude cualquier tipo de responsabilidad

la propia e i te be creo que están sinceramente con toda esta campaña que llevan desde hace un año año y algunos meses

institucional porque creo que están utilizando o pretenden utilizar a e i te be como chivo expiatorio de sus propios problemas y le reitero una vez más que e i te be lo único que hace es reflejar la realidad e i te be no es culpable de los problemas que puedan tener ustedes o nosotros o cualquier otro grupo político social o económico de esta sociedad y de este mundo son notarios de la actualidad

la convocatoria pública de empleo que tanto la critican

dicen que ustedes intentaron un acuerdo cuando estaban en el gobierno según fuentes sindicales propusieron sacar a concurso menos de los cuarenta y nueve puestos que actualmente se han sacado y por cierto sin ningún tipo de compromiso a favor del euskera

fijos que los que se han sacado en esta convocatoria pública de empleo menos de cuarenta y nueve menos entonces con que autoridad moral critican ahora la convocatoria pública de empleo que acaba de terminar que ha planteado más puestos fijos que ustedes y con exigencias naturales y lógicas en relación al euskera

plantearon cuando mandaban algún estudio estructural de plantilla

que no lograron un acuerdo porque la parte sindical no estaba por la labor en función de la propuesta que realizaron y alguien podría decir no me extraña pero si eso fue así señora mendia por qué no reconocen que ahora parcialmente sí se ha llegado a un acuerdo

y sin embargo lo critican eso de una manera furibunda

esa postura incoherente hipócrita

por ahí va hablan de abismo en relación a las audiencias pero

del dos mil catorce con un trece por ciento siendo dos mil trece un trece coma uno cómo calificarían obtener cuando ustedes estaban en el gobierno en el dos mil diez un doce coma uno y en el dos mil once un once coma tres abismo no sería no sé las cataratas del niágara o alguna cosa así por favor un poco de mesura un poco de proporción

el tiempo como he prometido voy a efectivamente no se preocupe señor maneiro sin abrumarle con datos excesivos que usted le considerará no creíbles pero efectivamente la sociedad vasca podemos afirmar con rotundidad que aprecia a e i te be

es el primer grupo de comunicación de euskadi ha logrado reconocimientos

esa gestión que tanto se critica ha sido reconocida

la ciudadanía vasca valora con un siete coma dos sobre diez el prestigio social de e i te be si le preguntamos

dice que es un medio de comunicación que sea veraz y creíble un catorce por ciento opina que deben de primar

y el resto se fija atributos como la claridad la comprensión

los servicios informativos obtienen un siete coma cuatro sobre diez y los programas de actualidad y opinión se acercan al siete no olviden que

primer grupo de comunicación y etb es líder en informativos cosa que no ocurría antes y eso es la ciudadanía que elige

apreciados respétenla respeten su profesionalidad

colocar en el tejado del gobierno una pelota sobre algo sobre un problema que la inmensa mayoría las dos terceras partes

necesario y urgente solucionar hoy no sé si por producto de haber repetido con una estrategia no correcta

vamos a rescatar esa pelota al gobierno y la vamos a trasladar a este parlamento a nosotros a los socialistas

sería responsabilidad absoluta de aquellos que han planteado la cosas con estrategias exclusivamente partidistas y no

de mejorar el servicio y de mejorar la gestión de e i te be no con la estrategia de hacer cumplir con el mandato de esta cámara

particular consideraríamos un error que esta cámara insisto no mantengamos en el tejado del gobierno este

es el único responsable de que se cumpla el mandato que se cumpla lo que aquí se decidió el día cinco de febrero

usted se ha reiterado aquí en que

se reafirma en lo que se aprobó el día cinco yo tengo la traducción

ya hubieran hecho la salvedad correspondiente y lo que ustedes dicen en su enmienda a la totalidad

lo que este pleno en la resolución que este pleno aprobó el pasado cinco de febrero al expediente de regulación de empleo yo no sé si usted está de acuerdo en esto y también el otro apartado importante

de la directora en cualquier caso nosotros vamos a seguir apostando y vamos a seguir afirmándonos en lo que dijimos el cinco de febrero el cese de la directora de e i te be

mire yo le pediría que no permita que portavoces del grupo que apoya a su gobierno mantengan discursos arrogantes discurso que en virtud de que consideran han decidido que la dirección de e i te be lo hace bien tiene que seguir igual

le ruego que no permita que portavoces del grupo que apoya a su gobierno hagan valer

para concluir que el resto la opinión del resto de los grupos de esta cámara no sirve para nada le ruego señor lehendakari que usted no permita

no permita discursos complacientes de portavoces del grupo que apoya a esta cámara

en esta cámara que tiene que ser debatida en esta cámara están haciendo

un discurso absolutamente arrogante y absolutamente complaciente que creemos que no le favorece absolutamente para nada a la gestión suya a su gestión como lehendakari y a la de su gobierno nosotros señor lehendakari le pedimos que el gobierno cumpla lo que este parlamento

cinco de febrero eso en primer lugar y en segundo lugar le pedimos que tome en consideración el debate que nosotros hemos propuesto hoy aquí

sobre el futuro de e i te be que lo tome usted en cuenta que lo tome en cuenta y que lo ponga en valor porque creemos que esa es la fórmula que permitirá que e i te be siga siendo un medio público al servicio de toda la ciudadanía vasca señor lehendakari

y pongamos a trabajar sobre él sobre la solución

público vasco y también le pediría señor lehendakari que a la dirección de e i te be le recomiende

lo censure como hizo ayer mismo en el teleberri de la segunda edición de la tarde donde se obvió absolutamente este debate que los socialistas habíamos planteado y que creemos que es necesario

la solución a un problema importante que tenemos sobre el medio

gracias señora presidenta muy buenos días y gracias a la cámara por haber posibilitado el cambio

la proposición de ley que plantea el grupo popular tiene su origen en el anuncio que conocimos el pasado mes de agosto

trasladaba la noticia de que las ayudas a la conciliación de la vida familiar y laboral

en ese mes de febrero y que por tanto todas aquellas solicitudes que se plantearan a partir de esa fecha no contarían con la ayuda a la conciliación de la vida familiar y laboral en ese mes de agosto pudimos comprobar cómo una de las ayudas

recogidas en la ley de apoyo a las familias no iba a contar con los recursos suficientes

pudieran ser atendidas todas las solicitudes que se presentaran o que se plantearan ante el gobierno vasco

estamos hablando de unas ayudas las ayudas a la conciliación de la vida familiar y laboral que cumplen una doble función

aquellas personas que tienen menores o personas mayores a su cargo

o puedan contar con otras personas que les puedan ayudar y para eso se puedan tener

llevar a cabo esto y por otro lado también y puesto que la mayor parte de las personas que se acogen a estas ayudas son mujeres estamos hablando también de

estamos hablando también de igualdad de oportunidades para las mujeres para aquellas mujeres que tienen una vida laboral que a la vez quieren compatibilizar con su maternidad puedan hacerlo con la ayuda

es decir ese doble objetivo que cumplían esas ayudas que de una manera unánime en este parlamento aprobamos en el año dos mil ocho

en ese mes de agosto conocimos que solo la cantidad consignada en los presupuestos llegaba hasta el mes de febrero en ese momento nuestro grupo

al gobierno qué había ocurrido porque ya sabíamos lo que había ocurrido en el dos mil catorce pero queríamos saber qué había ocurrido en el año dos mil trece la respuesta del gobierno fue que en el año dos mil trece

que no se atendieron en el año dos mil catorce dieciséis mil casi diecisiete mil las solicitudes no atendidas

hace poco el mismo día en que el gobierno anunciaba un nuevo recorte en las ayudas esta vez por hijos el mismo consejero anuncia que las ayudas a la conciliación de la vida familiar y laboral no llegarán más allá del mes de abril

en esta misma tendencia es decir la tendencia del recorte porque lo que sí es evidente es que el gobierno no está consignando los presupuestos suficientes las cantidades suficientes para atender a una demanda

se está quedando sin poder atender llegados a este punto el grupo popular más allá de la crítica

evidente que hacemos a este gobierno porque lo que demuestra a este gobierno no consignando los presupuestos suficientes es que no está atendiendo a uno de los problemas estructurales que tiene el país vasco uno de los retos que tenemos en el país vasco como están demostrando los sucesivos estudios

esos estudios nos plantean una fotografía para el año dos mil veinticinco es decir a la vuelta de la esquina la que nos dicen que el veinticinco por ciento de esa sociedad en el año dos mil veinticinco será mayor de sesenta y cinco años esa va a ser una realidad

y en ese escenario tendremos que plantearnos cómo vamos a mantener el estado de bienestar cómo vamos a mantener las estructuras que poco a poco y con gran esfuerzo se ha conseguido y la calidad de vida de la que disfrutamos en el país vasco

a diez años vista y es necesario replantearse como una de las prioridades

a esas cifras a esos escenarios que se nos están planteando creemos que la ley de apoyo a las familias creemos que las medidas que allí se recogen

las ayudas por nacimiento sino también a la conciliación de la vida familiar y laboral son una herramienta útil

herramienta útil sin la cual probablemente los datos de natalidad que tenemos ahora serían mucho peores porque lo que estamos posibilitando con esto es que aquellas

un hijo lo puedan hacer esta es una realidad a la que nos enfrentamos en el día a día y lo que tenemos que hacer más allá

a este tema creo que lo que tenemos que pensar es en clave país qué sociedad queremos construir qué sociedad queremos tener en ese año dos mil veinticinco que como les digo está a la vuelta de la esquina la propia ley de apoyo a las familias

estas ayudas no deben ir hacia atrás no deben sufrir el retroceso que están sufriendo los últimos años

de esa convergencia con europa esa europa dos mil veinte que debe ser el objetivo de euskadi creo que un objetivo irrenunciable y mucho más para la sociedad vasca

encontrar para que esas ayudas a la conciliación de la vida familiar y laboral no estuvieran al albur de las decisiones del gobierno vasco

porque en una situación de insuficiencia presupuestaria es decir de déficit presupuestario por donde empiezan a recortar es por las ayudas

y creemos que deja de manifiesto cuáles son las prioridades de este gobierno

las ayudas por hijo se van a reducir vemos también cómo este tema de la conciliación de la vida familiar y laboral se reduce

en un espíritu de querer contribuir a dar una solución creímos que había una fórmula que es la que también está recogida en la propia ley de

tienen carácter de derecho subjetivo de esa manera están blindadas quiere decir que el gobierno vasco tiene la obligación de atender todas las solicitudes que se produzcan

las ayudas a la conciliación de la vida familiar y laboral no tienen ese carácter de derecho subjetivo y esto es

lo que propone el grupo popular en la modificación de la ley que estas ayudas a la conciliación de la vida familiar y laboral también tengan el carácter de derecho subjetivo porque fíjense este gobierno realmente sin esta modificación

a esas peticiones a esas solicitudes de ayuda porque una cosa que no se cuenta es que el crédito de esas ayudas

hoy ya podría tomar la decisión de ampliar ese crédito y por tanto

pero no se hace y no se hace por una decisión por la voluntad de este gobierno de no recortar en otros lados de no atender

que esperen al año que viene que entonces ya veremos si se les puede ayudar mientras tanto lo que tenemos que pensar es en esas mujeres fundamentalmente mujeres

y han acordado una reducción de jornada pensando que van a tener esa ayuda del gobierno

o esas personas también que tienen mayores a su cargo que van a contar con una ayuda y que en este momento se les dice que no la van a tener

que un gobierno eso es lo que tiene que tener en cuenta a esas personas

por el hecho de que este gobierno haya decidido que no va a haber esas ayudas porque la decisión es la de cerrar la persiana

por eso yo apelo a esta cámara a los grupos parlamentarios a que más allá de los planteamientos

compartamos la necesidad de que si hay una serie de ayudas si esta cámara decidió en el año dos mil ocho dotarnos de una ley con una serie de ayudas que mantengamos esas ayudas que hagamos esa modificación para que esas ayudas también tengan ese carácter de derecho subjetivo

que se quieren acoger a estas ayudas planificar su vida laboral en función de esas ayudas y que se lo permitamos porque creo

de las mujeres probablemente este fin de semana que se celebra el ocho de marzo

haremos unos discursos estupendos en post de la igualdad

pero luego a la hora de la verdad esas mujeres se encontrarán con que cuando necesitan la ayuda de la administración

se encuentran con que se les cierra la persiana y que no se atienden esas demandas por eso creemos que esta modificación que es una modificación muy sencilla que sería la de

podría contribuir a generar la seguridad de que todas las mujeres que soliciten esa ayuda

porque no se les va a poner la excusa de que no hay dinero muchas gracias

sí muchas gracias si nosotros vamos a votar que sí vamos a votar a favor de la toma en consideración propuesta que nos trae el partido popular porque pensamos que las ayudas a la conciliación de la vida laboral y familiar deben constituirse como derecho subjetivo y por lo tanto no dependan de coyunturas presupuestarias o de decisiones políticas económicas o presupuestarias restrictivas la propia ley de apoyo a las familias en su exposición de motivos resalta la importancia de la familia y recoge el papel

entre otras muchas funciones se hace necesario

el apoyo a las familias evolucionando de un mero

a un modelo asentado en el derecho subjetivo con políticas garantistas de derechos y proactivas es necesario por lo tanto garantizar que las ayudas faciliten tanto la creación inicialmente de una familia como el incremento de sus miembros

como colectivo así como especialmente la corresponsabilidad y la conciliación se torna casi imposible dotar de estas garantías cuando las ayudas

presupuestaria se necesita por lo tanto de un compromiso político de una voluntad real de defender y fomentar los aspectos sobre los que inciden las ayudas a la conciliación y desde luego la evolución demográfica nos lo exige

a los problemas que se nos plantean y que es necesario promover multitud de políticas públicas también lo es que la consideración de las ayudas a la conciliación como un derecho subjetivo es un paso imprescindible para lanzar hacia el modelo deseado

y la familiar y personal no se tornen incompatibles si no complementarias garantizándose así tanto la igualdad como el derecho al trabajo el derecho al cuidado

y familiar por todo esto nosotros vamos a votar a favor de la toma en consideración gracias eskerrik asko maneiro jauna aurkako txandan nork parte hartu nahi du

eskerrik asko los socialistas defendemos el derecho

y las instituciones deben garantizarla con servicios públicos y políticas que lo hagan posible

no es eso lo que se nos trae es una propuesta asistencialista no una propuesta de garantizar derechos alderdi popularrak denontzako laguntzak nahi ditu bai

y lo que proponemos los socialistas es que la ley nos garantice a todos ocuparnos de nuestras familias sin que se nos penalice la trayectoria

para eso las instituciones deben poner remedio y deben impulsar medidas de conciliación y también legales en el ámbito del trabajo

y eso es exactamente lo contrario a lo que ustedes han traído hoy a esta cámara y además es justo lo contrario de lo que propicia la reforma laboral del partido

y lo que se necesita es que cuando haya ayudas el gobierno las ponga en manos de los solicitantes cuando se necesitan y no diez meses después

para atender a nuestros hijos por eso son necesarias las leyes y para ello son necesarios los servicios sociales que permitan esa conciliación

con ayudas se arregla con políticas públicas con colegios con horarios flexibles

con la ley de dependencia desarrollándola y no frenándola

que permita trabajar y atender a los familiares al mismo tiempo y también con ayudas que una vez de que se conceden y se reconocen se otorguen y no se retrasen meses y meses como está haciendo su gobierno señor urkullu los socialistas hemos sido

del estado social y de los derechos sociales de las pensiones de la sanidad y de la educación aquí en euskadi y en españa y ahora toca sentar

del estado de bienestar el de la protección social con servicios sociales y políticas que garanticen el derecho a la conciliación familiar al cuidado de los mayores y de los más pequeños

y favorecer que se atienda desde los servicios públicos a los padres y madres que tengan los hijos que deseen y atiendan a sus familias sin temor a perder su empleo ni su bienestar

en quienes más han sufrido los efectos de las políticas del partido popular en los parados que no tengan que elegir cuidar sus hijos o ir a formarse para encontrar un empleo en los trabajadores que han visto rebajados sus salarios o en las familias monoparentales que realmente están sufriendo más los efectos de la crisis y que mayoritariamente son mujeres

que no tengan que esperar eternamente para ejercer su derecho a la maternidad o a la paternidad las ayudas deben garantizar esa conciliación en esas circunstancias

que es la creación de un fondo de cohesión social un fondo que el lehendakari firmó con el partido socialista lehendakariak fondo honekin konpromisoa

zerga sarrerak handitzen ditu eta pentsioak ordaintzeko gizarte segurantzan kotizante gehiago lortzen ditu y esa es la apuesta de los socialistas el partido popular

empobrece a los trabajadores que complica la conciliación

en la universalización esperamos que esta reflexión también que tiene abierta el gobierno vasco sobre esta cuestión no se haga sobre criterios solamente

de extensión y garantía de derechos esperemos que asuma su propio compromiso y empiece a poner las bases que garanticen ese derecho porque ya vamos tarde pedimos desde esta tribuna que no se retrasen más tiempos las ayudas

para la conciliación nos hemos abstenido porque nuestro modelo no es el del partido popular claramente porque la propuesta que trae hoy aquí el partido popular ni siquiera la asume porque si la asumiría

alavés competente del ramo lo hubiera extendido a todos los españoles y no lo ha hecho porque quienes piden más controles para otras ayudas ni siquiera

a estas ayudas al control de estas ayudas y porque es una propuesta que sirve solo y la proponen solo para tapar las consecuencias de tres años de recortes

guk ez dugu uste las ayudas económicas a las familias bien por nacimiento o para la conciliación son un mero complemento a las políticas de natalidad

no son tan determinantes a la hora de decidir tener más hijos la planificación y el desarrollo del propio proyecto familiar vienen determinados por muchos más factores culturales apoyos del entorno familiar y comunitario relacionados con las

económicos laborales a nuestro entender la modificación de la naturaleza jurídica de las ayudas para la conciliación pasando de su naturaleza subvencional al derecho subjetivo no modificará la baja tasa de natalidad existente en euskadi por eso el gobierno vasco está inmerso en un proceso de reflexión para evaluar hasta qué punto

por muy derecho subjetivo que están las primeras son efectivas a la hora de promover la natalidad y tal y como ha sido anunciado en varias ocasiones las conclusiones de dicha amplia reflexión concluirán

a favor de la natalidad y de apoyo a las familias de lo expuesto en diversas jornadas y cursos se desprende que es en el segundo hijo o hija

señalan que hay familias que estarían dispuestas a tener un segundo hijo o hija pero que las dificultades económicas y del entorno socio laboral les disuaden de ello

por lo que parece más razonable hacer una revisión

en las rentas más bajas la condición o no de derechos subjetivo de las ayudas a la conciliación no ofrece ni mayor efectividad ni mayor justicia

actuar sosegadamente implementando medidas eficaces que produzcan los efectos deseados

a debate la adecuación del decreto regulador de las ayudas de emergencia social para dar respuesta a aquellas personas que teniendo justificada la necesidad se están quedando fuera

económica ha destapado era voluntad de mi grupo haber debatido también hoy y de manera urgente

para atender los casos de pobreza energética que no están siendo cubiertos por las ayudas de emergencia social para que esto fuera articulado mediante convenio con las organizaciones sociales pensábamos que la urgencia estaba justificada porque vivimos meses de frió invierno

pero ni el partido nacionalista vasco ni el partido popular ni eh bildu han entendido que debatir sobre cómo articular una ayuda para las personas

decía que la crisis económica nos ha traído a euskadi una nueva realidad y nuevas situaciones de necesidad esto no lo décimos nosotros lo dicen los numerosos

el estudio que realizó el cis por encargo del departamento de empleo y políticas sociales

la encuesta de pobreza y desigualdades también realizada en dos mil catorce y que presentó el consejero aburto en este parlamento el seis de noviembre

y los informes de las propias organizaciones sociales de todos ellos un notable incremento de las situaciones de ausencia de bienestar y de riesgo de pobreza los datos hablan por sí solos a finales de dos mil catorce

ausencia de bienestar sí un veintidós coma siete por ciento de lo población vasca

están en riesgo de pobreza la comunidad autónoma vasca presenta en estos momentos una tasa de desempleo del dieciséis coma dos por ciento y las nuevas contrataciones se están precarizando

preocupantemente la temporalidad y la parcialidad la situación de quienes están sin empleo es alarmante el cincuenta y cinco coma tres por ciento de personas

es evidente señorías que existe más dificultad para llegar a fin de mes para afrontar los gastos de primera necesidad y los asociados a la vivienda como los recibos

nuestro sistema de protección social que lleva más de veinticinco años en funcionamiento ha amortiguado en parte los efectos de la crisis económica aun así los estudios anteriormente mencionados evidencian que más de ciento treinta y ocho mil hogares se ven afectados por procesos de exclusión social

se encuentran en exclusión severa aunque el dinero no es garante por sí mismo de la integración social sí reduce la intensidad de los problemas de exclusión lo cierto es que la precariedad laboral implica contratos discontinuos con salarios más bajos

en muchos hogares vascos la mayor parte de estos hogares son de tipo unipersonal o nuclear con hijos y quiero resaltar que la mayor vulnerabilidad social la sufren los hogares con menores de edad o con al menos algún miembro

señorías no me negaran que ante la coyuntura actual parece importante que nos preocupemos en conocer cuántas personas se encuentran en situación de vulnerabilidad y exclusión

acudiendo ayuda a lanbide y a los servicios sociales de base de los ayuntamientos en euskadi es evidente que la red de solidaridad institucional la familiar y la de las organizaciones sociales ha paliado los efectos de esta larga e inesperada crisis no obstante

el número de hogares que no cuenta con ayuda económica en momento de necesidad se ha incrementado y son ya tres de cada diez hogares los que se encuentran en situación de necesidad

estos datos nos deben llevar a la reflexión y al debate político para alcanzar un consenso en torno a los ajustes que necesita un sistema de protección social vasco y no al camino del disenso y de polémicas artificiales e interesadas sobre las ayudas sociales que de forma planificada se arbitran bajo espurios intereses electorales que no llevan más

este parlamento debe frenar esos embates interesados y no dejarse arrastrar por intereses electorales este parlamento debe reconocer que existe problema

padecen ausencia de bienestar un veintidós coma siete por ciento de la población vasca y ciento setenta mil están en riesgo de pobreza un ocho coma dos por ciento en una sociedad

hablamos de personas con serias dificultades para llegar a fin de mes

de las condiciones laborales y salarias y hablamos de personas que llevan demasiado tiempo en el paro y que han agotado

los socialistas hemos tomado nota de los datos relatados y que en lo fundamental son compartidos por todas las organizaciones sociales e instituciones

en que nadie que lo necesite se quede sin la solidaridad de todos por eso solicitamos que el gobierno vasco reforme el decreto cuatro barra dos mil once porque esta acción es un acto de gobierno depende de su voluntad y hoy el decreto de las aes está mostrando sus limitaciones este decreto

por lo que impuso unos estándares patrimoniales para acceder a estas subvenciones el tiempo ha demostrado que esos límites dejan abierta la puerta a la exclusión porque

una huerta en un pueblo una lonja que no se acaba de vender está restringiendo el acceso al sistema a personas con auténticas emergencias y que no tienen liquidez personas que tienen patrimonio que no pueden vender y que no tienen dinero para afrontar los gastos de primera necesidad y los gastos propios de la vivienda por eso proponemos que ese decreto

al de liquidez por supuesto con todas las cautelas que el gobierno considere para impedir que nadie se pueda aprovechar de este esfuerzo el pnv hablaba en su enmienda

el gobierno ya los ha hecho el propio gobierno trajo a este parlamento hace cuatro meses la última encuesta de pobreza y desigualdades y los datos son concluyentes los datos

sociales y las necesidades no pueden esperar no se pueden dilatar más termino mostrando el agradecimiento del grupo socialista a los grupos

por la cordialidad en las conversaciones previas y por el consenso alcanzado

que recoge ante todo una encomienda al gobierno vasco para modificar el decreto cuatro barra dos mil once con el fin de que

las personas que no cuentan con liquidez para atender esos gastos específicos que prevén y palien situaciones de exclusión social así como las nuevas situaciones de pobreza no cubiertas instamos al gobierno vasco a que dé los pasos necesarios

teniendo en cuenta sus propios informes y también los de las organizaciones sociales que ponen de manifiesto estas nuevas realidades y necesidades no cubiertas que conducen a la pobreza y a la exclusión social y también recogemos en el segundo punto que

las modificaciones de dicho decreto antes de su aprobación animamos también a los grupos no enmendantes a que se sumen a la aprobación de esta iniciativa y

esas necesidades de las personas ante las situaciones tan complicadas que están enfrentando por nuestra parte nada más eskerrik asko

erdibideko testua adostea por qué décimos que es un buen acuerdo porque el gobierno gracias a este acuerdo tendrá que modificar el decreto cuatro barra dos mil once el decreto como todos ustedes saben regulador de las aes

se trata de una ampliación de derechos se trata de llevar a más personas de atender a situaciones nuevas de pobreza

a las personas que hoy en día por el límite patrimonial a pesar de no tener liquidez no reciben las ayudas de emergencia social kalean eskatzen ari da

félix arrieta e iñigo calvo profesores de economía nos han advertido de que de las ciento setenta mil personas que se encuentran en desempleo en araba bizkaia y gipuzkoa

el sesenta y cuatro por ciento ya son parados de larga duración nos avisaban del riesgo real que existe de cronificación del desempleo y de la posibilidad

un desempleo estructurado nos decían que del paro de larga duración a la exclusión social hay un paso eta horiek

familias que necesitan las ayudas de emergencia social y no las reciben porque a pesar de no tener dinero suficiente para cubrir sus necesidades básicas a pesar de no disponer dinero en efectivo para pagar la cuota del prestamo hipotecario o para pagar

puede ser que tengan patrimonio que no pueden vender y por eso superen el límite establecido gracias al acuerdo que hoy firmamos el gobierno el departamento del consejero toña creemos que tiene un gran reto a partir de hoy le tocará analizar todos esos casos todas esas

y muchas más para ponerle remedio modificar el decreto y venir a este parlamento a presentar todas esas modificaciones antes de su aprobación durante el año dos mil quince una modificación de decreto que entre otras cosas implicará entendemos un aumento presupuestario para el año dos mil dieciséis porque si se van a paliar situaciones no cubiertas hasta ahora indudablemente

de manera importante ampliación de derechos

y paliar situaciones injustas con eso nos quedamos aurrerapausoa baina ez da behar dugun bakarra

eman behar ditugulako lo que hoy hemos puesto los tres grupos enmendantes sobre la mesa no es una solución que sea tampoco para

no es una medida que lo resuelva todo porque todavía queda mucho por mejorar en otros ámbitos de actuación y podríamos poner algunos ejemplos como las

conciliación laboral y familiar vivienda inserción social el funcionamiento de lanbide o lo doblemente vulnerables que somos las mujeres en todos estos casos tenemos que volver a hablar de la feminización de la pobreza porque las mujeres no trabajamos dentro y fuera del hogar

ni logramos un empleo en las mismas condiciones que los hombres y además nos insertamos laboralmente mucho más tarde que los hombres pero esa es otra pelea beste aldetik

ya nos vamos conociendo y seguramente que ustedes sospechan que lo volveremos a solicitar volveremos a pedirle al gobierno que habilite la partida presupuestaria suficiente

no vamos a renunciar a ello porque las previsiones ya nos indican que este año de nuevo

y otra vez serán los ayuntamientos los que tengan que volver a utilizar sus recursos

a esas familias que lo necesitan en la mayoría de los casos para pagar algo tan fundamental como los gastos de mantenimiento de vivienda en el dos mil trece

en el año dos mil catorce los ayuntamientos pusieron diez millónes de euros de su bolsillo cuando el gobierno vasco aumentó la partida en un nueve por ciento se tramitaron cuarenta y siete mil solicitudes que atendieron

gracias en parte al esfuerzo de los ayuntamientos aurrikuspenak ez dira onak eskatzaile gehiago jasoko dira

inguruan no nos cansaremos de repetir que tenemos un sistema de protección social referente tanto para el estado como para europa un sistema y eficaz aprobado por amplia mayoría y que a nuestro juicio

en la sociedad además como decían también los profesores arrieta y calvo de la universidad de deusto dicha inversión revierte en la propia economía de euskadi también hemos de reconocer que el sistema

en que ha de ser aplicado la larga crisis que hemos padecido ha supuesto un incremento muy importante en el número de usuarios y usuarias del sistema de protección personas que estaban en muchos casos en las antípodas de ser perceptoras de estas ayudas cuando se creó el sistema

a entrar en el mismo para poder subsistir por lo tanto compartimos con la señora sarasua la necesidad de adecuar la normativa vigente a las nuevas realidades

situaciones terribles que requieren respuestas distintas a las que se venían dando hasta la fecha

estamos de acuerdo en la existencia de nuevas realidades y necesidades por lo que estimamos necesario que todas ellas sean examinadas a fin de poder adecuar el decreto regulador de las aes a las nuevas demandas surgidas ha sido fácil como decían también

de la palabra llegar a un acuerdo con el partido socialista y con eh bildu porque en el fondo compartimos la importancia del sistema de protección que tenemos así como la imperiosa necesidad de adecuarlo a las nuevas realidades que están dejando fuera de su cobertura a mucha gente que lo está pasando francamente mal como creemos en la necesidad de modificar el decreto regulador de las aes como la mayoría de los grupos de esta cámara

en suprimir la necesidad de realizar un nuevo estudio y utilizar los ya existentes en aras a obtener un amplio consenso en la cámara que facilite dicha modificación

el gobierno está dispuesto a obtener los datos necesarios para conocer las nuevas realidades y demandas de los diversos informes existentes como pueden ser la encuesta de pobreza y desigualdades del dos mil catorce realizada a instancias del propio departamento

también se compromete a utilizar los datos de varios estudios elaborados a instancia del departamento de empleo y políticas sociales

con meridiana claridad la evolución producida en la demanda y necesidades de los perceptores y las perceptoras de las ayudas de emergencia social datu guzti hauek

txarren pasatzen ari diren pertsonen aldeko ekimena da gaur onartuko duguna en resumen el punto primero de la transaccional pide al gobierno que de los estudios existentes extraiga cuales son las nuevas necesidades y demandas de las

para poder realizar la modificación del decreto regulador en consonancia con las mismas además

que en ningún caso podrá ser efectivo en un plazo menor a nueve meses como bien conocen todos aquellos grupos que han tenido

insistimos la tramitación de los decretos son competencia única y exclusiva del ejecutivo no tienen por qué someterse al control previo de la cámara

y en deferencia a los grupos de la oposición mediante la transaccional hoy firmada

se compromete a explicar en la comisión de políticas sociales los cambios más significativos impulsados en el decreto regulador de las aes con anterioridad

evidentemente se escuchará la postura del resto de los grupos que no se verá vinculante para la aprobación de dicho decreto por su propia definición

que este compromiso de hoy es reflejo de la transparencia y buen hacer de este gobierno así como de su voluntad de acuerdo y de participación abierta besterik ez eskerrik asko

los diferentes portavoces salvo esto último que ha dicho la señora arregi

votaré a favor de esta transacción gracias eskerrik asko

a todos quería plantearles una cuestión que me parece fundamental los vascos que tienen necesidades como las que hoy estamos planteando en

uno es la renta de garantía de ingresos el otro son las ayudas de emergencia social son distintas fórmulas

muy comunes hay una diferencia sustancial y me gustaría empezar por abordar

la gran diferencia entre una y otra desde mi punto de vista y creo que también desde el punto de vista de los demás es que la renta de garantía de ingresos es decir solventar

a una persona se le diga usted no tiene acceso a la renta de garantía de ingresos porque dispone además de su vivienda habitual de otro pequeño inmueble de escaso valor patrimonial que le excluye esa modificación ese asunto en la renta de garantía de ingresos

sería primero un derecho subjetivo de todos los vascos en aquellas condicione y segundo sobre todo

los doce meses y en todos los ayuntamientos es decir si estas modificaciones que se plantean se introdujesen

sino en la normativa de la renta de garantía de ingresos tendríamos una situación absolutamente diferente por qué digo esto porque la opción que ustedes plantean de modificar los parámetros que definen las ayudas de emergencia social introduciendo

una de ellas ustedes dicen ahora mismo estamos excluyendo algunas personas que tienen además de su vivienda habitual otro

vamos a darle cobertura por las ayudas de emergencia social y yo me pregunto

por qué hacen ustedes eso por qué hacen ustedes esa cobertura a través de unas ayudas de emergencia social que el gobierno vasco todos los años no cumple para todo el mundo los doce meses qué pasa que aquí se pasa frio solo

dejó de pagar las ayudas de emergencia social en el mes de septiembre si no estoy

entonces lo que está sucediendo es que ustedes plantean vamos a mejorar el sistema de cobertura para no utilizar la renta de garantía de ingresos porque ustedes se han posicionado absolutamente en contra de una modificación de la norma de la renta de garantía de ingresos

pero se olvidan de una cosa la propuesta que ustedes plantean aquí es una propuesta que siendo muy voluntarista si a la vez el mismo día

no la incrementan en este momento lo que están diciendo es vamos a instar al gobierno vasco a que amplíe la cobertura en las ayudas de emergencia social para

por cierto asunto que debatimos en el último pleno y que todos ustedes votaron en contra llamándome de todo lo recuerdan ahora al día siguiente en el pleno siguiente aparece la pobreza energética pero ya no en la renta de garantía de ingresos aparece misteriosamente

ustedes saben que uno de los contenidos el artículo tres en concreto de la ilp que se está tramitando en este parlamento y que yo defiendo junto a mi grupo en el parlamento incorpora entre otros asuntos que se amplíen los supuestos de cobertura de la renta de garantía de ingresos a aquellas personas que además de su vivienda habitual tengan

lo sabían o no porque nos han llamado de todo por defender esto y resulta ahora que lo sacan ustedes en el debate pero yo tengo que destapar la olla porque este cocido que están haciendo ustedes hoy huele fatal huele fatal por una razón

en el caso en el que se apruebe esta iniciativa tal y como está planteada solo beneficiaría a aquellos ciudadanos de euskadi de ayuntamientos o ricos o grandes sí así de claro

los ayuntamientos con menos recursos y los ayuntamientos más pequeños no tienen capacidad presupuestaria para hacer los deberes del gobierno vasco cuando se olvida de dotar económicamente las aes y ahí tenemos que estar de acuerdo

u otros ayuntamientos no complementan he dicho ejemplos al azar

en algunos casos en la mayoría de ayuntamientos de euskadi los presupuestos municipales

de las ayudas de emergencia social con su propio presupuesto cuando el gobierno vasco dice

entonces su propuesta esto de como hemos dicho que no al debate importante que es introducir el derecho subjetivo

porque parece que ahora ustedes empiezan a cambiar el discurso ahora nos dicen no efectivamente resulta esto que están diciendo

y lo que muchos vascos están firmando en una ilp que en su artículo tres incorpora un punto que es básico en el que parece que ahora ustedes reculan y estamos de acuerdo que es efectivamente no se puede dejar tirada a una persona

otro patrimonio ahora se dan cuenta después de seis meses ahora se dan cuenta de esto en vez de decir pues lo siento nos hemos equivocado cuando llegue la ilp en esto

no lo hacen así dicen no de la rgi que es un derecho subjetivo y que llega a todos los vascos aunque vivan en un municipio con pocos recursos y aunque sea un ayuntamiento pequeño no lo hacemos

que solo llegan los doce meses en ayuntamientos como el de vitoria u otros que tienen capacidad no se ría porque es que hay muchísimos ayuntamientos en gipuzkoa

pero que no tienen la capacidad de poder contribuir a que sus ciudadanos

reciban del ayuntamiento esas prestaciones entonces por qué hacen esto pero no es mejor decir nos hemos equivocado en esto al menos en esto usted tenía razón o ustedes tenían razón mire hay muchísimas cosas de sus propuestas en las que no coincidimos en nada en el fondo o en las formas yo estoy dispuesto a hacer ese debate llegará tarde o temprano y cada uno tendrá que hacer su propia autocrítica asuntos de la ilp que estamos tramitando que son de sentido común y que ustedes hoy ponen de manifiesto aquí efectivamente por fin se dan cuenta

que por tener un segundo patrimonio ridículo a veces invendible una herencia que no se puede materializar no se puede vender una huerta

pero ustedes deciden no tenemos demasiado orgullo para decir nos hemos equivocado en esta parte mire

teníamos razón en otras igual no en el fondo

pero no aplican la medida necesaria hacen un acuerdo y dicen vamos a modificar las aes

garantizamos hoy a nadie que haya más dinero o sea que mañana cuando algunos lean en los medios de comunicación el gobierno vasco ampliará los supuestos para que efectivamente como estábamos pidiendo algunos las personas con un patrimonio escaso además de la vivienda habitual no se queden tiradas preguntarán bueno

lo estoy haciendo hoy les tendremos que decir que no que no que esto solo es si los ayuntamientos de buena voluntad se prestan a ello o sea la cuenta la cuenta de la factura de hoy a los ayuntamientos lo que pasa es que no todos los ayuntamientos pueden además no quieren hay ayuntamientos como el de bilbao que es un ayuntamiento rico y grande que no hace esto y cuando el gobierno vasco termina con las ayudas de emergencia social dice se acabó te cierro la ventanilla que tienes frío pues esperas a enero

eso hace bilbao pero en todo caso en todo caso me pueden explicar porque yo pretendo hoy no hablamos de nada más personas con patrimonios pero con escaso patrimonio además de la vivienda habitual espero que no tengamos otro debate distinto pero yo me pregunto por qué no lo hacemos en la rgi que es para todos los vascos y los doce meses por qué

sin el dinero del gobierno vasco que sabemos que ahora es más cobertura con el mismo dinero es decir

o en julio o sea que los ayuntamientos que podamos o queramos tenemos que poner más dinero y hacerlo para cubrir un supuesto simplemente porque algunos no quieren decir nos hemos equivocado en esto desde luego tenía razón no podemos seguir excluyendo

a personas que tienen además de su vivienda habitual un escaso patrimonio adicional de poco valor por qué no

y cambiar de posición en un momento dado pues yo lo digo yo lo digo y no tengo ningún problema

pero claro después de la que han montado de la que han armado de lo que nos han dicho se ríen pero es para llorar
se ríen pero es para llorar isiltasuna mesedez isiltasuna eta maroto jauna amaitzen joan porque solo se puede reír una persona que no se haya leído

en su artículo tres señores pone exactamente

mesedez mesedez amaitzen joan maroto jauna denbora agortu zaizu sí se trata simplemente de poner voluntad
al asunto y abordar el asunto donde se debe maneiro jauna isiltasuna que es en la renta de garantía de ingresos y no

señor maroto a usted le duele el dinero que no le llega a su ayuntamiento para poder

que justifican su necesidad de las ayudas de emergencia social evidentemente y también a los ciudadanos a los que usted está cuestionando y que tienen la necesidad

porque eso es lo que está pasando y nosotros no tenemos que salir aquí a reconocer errores tenemos que salir aquí a hacer lo que estamos haciendo a hacer propuestas a hacer debates

como siempre ha existido en torno a los temas sociales entonces

y usted por qué no plantea lo que usted plantea para las ayudas de emergencia social

es que hay que saber tener el billete de ida y de vuelta

no hay que cuestionarlas y resulta que las ayudas que gestiona el gobierno vasco las cuestiona usted pues mire eso no es así eso no es así evidentemente la portavoz del partido nacionalista y la portavoz de eh bildu han apelado a una buena comparecencia que me hubiera gustado que hubiera estado usted aquí que vino la universidad vasca a comparecer para explicar en la economía vasca como revierte la inversión

y sabe lo que nos dijeron que la diferencia de todo lo que está pasando en el país vasco y la diferencia que nos marca con españa con el resto de las comunidades es precisamente por la inversión que se está haciendo en las políticas de protección social en las políticas sociales ya dijeron que el riesgo real que existe en esta sociedad es la cronificación del desempleo

económica esta cuestión había que abordarla y explicaron efectivamente que esa mejor situación socioeconómica y de empleo en euskadi con respecto al resto de españa era precisamente por la existencia de un sistema de protección social junto

aún así ya dijeron ciento setenta mil ciudadanos están en desempleo

de parados son de larga duración y algunos ya no cobran prestación de desempleo la mayoría no cobran prestación y han tenido que recurrir

vasca por lo tanto nadie dice que tengamos que hacer ajustes y mejoras en la gestión evidentemente ya lo hemos dicho los tiempos son los que son y nadie se esperaba que esta crisis fuera tan larga y que tuviera esas causas y esos efectos que están teniendo los ciudadanos por eso si usted quiere hablar de ajustes si quiere hablar

sin poner en el foco de la polémica precisamente a las personas más vulnerables a esas que no le pueden a usted rebatir

señor maroto es así es así además me gustaría decirle que como alavés se debiera de preocupar por la situación que en este momento está pasando la provincia de álava y por esa necesidad que tenemos de esas políticas sociales más que el resto de provincias tenemos veintisiete mil novecientos diecinueve parados recién dato de febrero de esos

en dos mil doce había doce mil novecientos veinticinco personas cobrando el subsidio de desempleo en dos mil quince

de los contratos realizados en el pasado mes el noventa y tres por ciento es a tiempo temporal inferior a tres meses este

y muchos de ellos cobrando cuatrocientos cincuenta euros mensuales ese es el problema que tenemos que vencer esas son las políticas públicas que tenemos que afrontar eso es lo que tenemos que conseguir señor maroto y desde luego que si nos quiere encontrar en el disenso no lo va a conseguir pero nosotros sí queremos llegar al consenso muchas gracias

eskerrik asko berriro no teníamos intención de tomar la palabra en el segundo turno porque teníamos un acuerdo firmado por los tres grupos enmendantes pero después de las perlitas que nos ha soltado el señor maroto pues tenemos que decir algo

sí que no ha extrañado que hoy no llevase el debate otra portavoz que lo suele

casi siempre tenemos el mismo sentido del voto nos ha extrañado que hoy lo llevase el señor maroto y ahora hemos visto el porqué ya sabemos que los ayuntamientos

en mi primera intervención se tienen que hacer cargo de aumentar esa partida diez millónes de euros el año pasado nos parece

y hoy en nuestra enmienda a la totalidad estaba recogido pero también he dicho que lo hemos quitado porque hemos creído que este es un acuerdo y como la propuesta no era nuestra era una enmienda a la totalidad volveremos a traer el debate

espero y deseo que lleguemos a un acuerdo está claro también creemos que si se trata como hemos dicho y le hemos dicho al señor toña de ampliar derechos seguramente

y sino aquí nos va a tener una y otra vez como nos ha tenido pidiéndoselo solicitándoselo

el discurso ni lo hemos cambiado lo que pasa es que usted no nos entiende creo que es que usted

o manipula porque decir que parece que estamos de acuerdo en torno a la ilp que usted está defendiendo en la calle porque aquí todavía no ha llegado

nos ofende ha vuelto otra vez a mezclar la pobreza energética con las

porque precisamente es un gasto subvencionable en las ayudas de emergencia social ya sabemos que con eso no se termina de paliar la pobreza energética pero es una pequeña medida

para lo que se utilizan las aes es para pagar gastos de mantenimiento de vivienda créditos

se quede en la calle y pierda su vivienda por eso no vamos a admitir no vamos a admitir que nos hemos equivocado porque creemos

es malinterpretarlo malinterpretar a propósito nuestras palabras hoy aquí hemos conseguido

un buen acuerdo un buen acuerdo que amplia derechos que amplia coberturas usted solamente se ha referido al límite patrimonial en la enmienda pero hay mucho más

y por eso no lo ha nombrado nosotros sí por eso está recogido en esa enmienda y hoy mientras aquí hemos firmado un buen acuerdo usted sigue en su microgune en su micro nebulosa con su sillón a la alcandía en la rgi

porque parece que no ve mucho más allá no ve mucho más allá hoy hemos vuelto otra vez a escuchar el fascículo tres o el capítulo tres de su libro porque ha venido a vender su libro que podríamos titular por ejemplo cómo llegar a ser alcalde de gasteiz y cargarme los derechos sociales en el intento por ejemplo otra vez

aquí otra vez de nuevo otra vez ha llevado el debate donde quería

tenemos un buen acuerdo tenemos un buen acuerdo y en eso nos quedamos usted

y su nariz eskerrik asko eskerrik asko